señores señoras consejeras confieso que voy a intentar

y comenzaré haciéndolo intentando aportar algo de información porque para

con cierto rigor sobre algo es importante también aportar toda la información y toda la información pasa por contar

o la realidad la dimensión de la realidad del contenido va a suceder el acto que se va a celebrar en bilbao

efectivamente bajo el título del global forum spain y organizado el ministerio de economía y competitividad en colaboración con el club de emprendedores en bilbao y bajo el lema de la estabilidad al crecimiento

los lideres empresariales fondos de inversión internacionales nacionales para hablar del nuevo modelo de crecimiento español

qué hacen las empresas cómo trabajan

cuáles son sus dificultades cuáles son sus grandes retos en definitiva

quién va a estar allí además del alcalde de bilbao

del lehendakari el presidente del gobierno y de su majestad el rey ahí va a acudir efectivamente christine lagarde que como ustedes saben es la directora gerente del fondo monetario internacional va a acudir el presidente del eurogrupo

va a estar el presidente del banco europeo de inversiones va a estar el presidente del ico

el día después la consejera tapia en el foro nueva economía va a estar el presidente ejecutivo de telefónica empezamos con las empresas que van a estar allí

el presidente del bbva el presidente del grupo inditex

el presidente técnicas reunidas el presidente de talgo el presidente de gestamp

de siemens el vicepresidente de compras de volkswagen el presidente de renault españa el presidente de kudelski además estos son los que van a estar interviniendo los que van a compartir su modelo empresarial

su modelo de futuro su visión de cómo seguir avanzando pero además también van a comparecer ahí van a estar allí centenares de empresas de empresarios vascos

buscando como pueden porque el aforo es limitado una presencia insisto centenares de líderes empresariales vascos la realidad y ya lo he comentado en alguna otra ocasión

es que vivimos en un mundo en continúa transformación en otras ocasiones hemos hablando de las transformaciones políticas que está experimentando el mundo que está experimentando europa

no son ajenas a las transformaciones económicas pero el mundo se está transformando

y claro vivimos en un país que ha puesto en marcha importantes reformas para algunos catalogadas en sentido negativo pero importantes

con el esfuerzo de los ciudadanos con el objetivo doble que es por un lado salir de una crisis económica en la que llevamos más de seis años pero lo que es más importante para adaptarse a ese mundo del que les hablo que está en continua transformación y que nos exige entre otras cosas ser más competitivos más eficaces y resulta que bilbao el lunes va a ser el centro económico

pero va a ser el centro económico europeo va a acoger sin duda alguna el lunes el acontecimiento económico y empresarial

llama la atención sorprende la reacción de algunos por no decir del resto en esta cámara no sorprende

porque aquí nadie les puede negar que oculten su posición y su modelo económico y social

es otro es otro completamente diferente es uno diametralmente diferente

la mayoría es un modelo económico y social que tiene como referencias y lo hemos dicho en alguna otra ocasión y como sé que les gusta se lo repito tiene como referencias

la venezuela de maduro la cuba de los castro

es decir como todo el mundo sabe como todo el mundo sabe modelos de desarrollo económico y social de acreditado éxito

y en el presente donde por cierto los ciudadanos viven unas cotas de bienestar social

inigualables ese es el modelo que ustedes defienden y que lo reiteran aquí una y otra vez con soflamas

pero eso es lo que ustedes defienden pero no sorprende como les decía que estos señores vengan a ponernos esos modelos económicos y sociales de acreditado éxito como la alternativa a lo que nosotros defendemos el resto entiendo cada uno con sus matices defiende

y aquí me voy a detener para también intentar echarle una mano al señor lehendakari sorprende que el resto en relación a un acto a un encuentro de estas características que va a poner a euskadi en el mapa

y debe de poner en valor a las empresas vascas que insisto están insistiendo y buscando hueco para poder acudir allí que por cierto son las empresas vascas las que crean empleo

cierto aldeanismo político si me permite la expresión que va sin ánimo peyorativo de algunos de los que han intervenido porque hemos pasado desde ya me gustaría que contara señor lehendakari el programa de upyd

lo mal que lo hacen y nosotros que somos muy sociales a diferencia de ellos

y sorprende sobre todo la reacción del partido nacionalista vasco sorprende poderosamente

días semanas poniéndose de perfil ante un evento que es objetivamente bueno para euskadi ante un evento que es objetivamente bueno para nuestras empresas sorprende cómo hace pocas horas el portavoz del gobierno vasco prácticamente decía a mí no me pregunten por esto que yo no quiero saber nada que esto me quema sorprende su reacción

sus argumentos ante los de bildu casi como pidiéndoles perdón por la presencia del lehendakari casi como intentando justificar y casi como intentando sí

vaya a estar en ese acto sorprende que el partido nacionalista vasco viva de esta manera

con un acto que es objetivamente bueno y que nuestros empresarios y ustedes si no lo saben lo deberían de saber y seguro que el lehendakari lo sabe creen que es un acto tremendamente positivo no importa que haya sido a instancias del gobierno de españa o que haya sido promovido por el partido popular de euskadi

bueno para euskadi que es una oportunidad para los vascos que es una oportunidad para nuestro tejido empresarial

lo que hacen nuestras empresas que son quiénes generan empleo

que son quiénes ven en este acto y en este foro una oportunidad para traer inversión a euskadi y el lehendakari lo que tiene que hacer y para eso le echamos una mano y le ayudamos

aportar certezas aportar una euskadi que es la de nuestros empresarios esa que es atractiva para que la inversión venga a esta tierra y yo no entiendo por qué a ustedes les preocupa y por qué usted sale aquí poco más o menos que encogida perdóneme la expresión prácticamente a pedirles disculpas a estos señores es algo inédito

pero si es un evento de proyección internacional si es un evento que nos sitúa en la modernidad que nos sitúa precisamente en el tren de la reflexión y del debate que está habiendo en el mundo

si es un evento que va a servir a nuestras empresas para interconectarse con otras empresas y para poder contar lo que hacen y para poder aprender por qué a ustedes les da

porque no se puede explicar desde otra perspectiva su actitud muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

españa de la estabilidad al crecimiento me parecería motivo más que suficiente para que un gobierno vasco dirigido por una formación nacionalista pudiera tener algo que objetar me parece también que ha señalado muy bien cuáles son los objetivos y en cualquier caso le diré no he citado todos los asistentes porque ya lo hice en la interpelación cierto que como las interpelaciones tampoco gozan

en ese momento cuando yo también hice la retahíla esta de enumeración de todos los lustrosos invitados que van a venir pues no le pilló aquí pero en cualquier caso

de algunas se pueden extraer cosas interesantes de otras incluso podríamos coincidir en alguna crítica pero le diría que seguramente me conformaría

al menos una décima parte de digno de lo que es pepe mujica en uruguay con eso nos valdría pero me parece que ese no es el camino de la modernidad que el estado español preconiza y lidera y

yo creo que he hecho una intervención bastante medida en la que he cuidado muy mucho mis palabras porque no sé por qué pero parece que tiene que haber una secuencia ineludible para que acabemos en un enfrentamiento personal que a mí desde luego me interesan más bien poco

y si yo estoy en desacuerdo con las ideas se lo diré una y tantas veces así le moleste como que no

caso le diré que yo no he empleado palabras que entiendo que podrían haber sido calificadas de insulto digo todo esto por lo que ha dicho de insultar porque usted ha venido con una lectura apriorística de lo que creía que iba decir eh bildu y en función de ello nos ha dicho

mal yo me he referido a una serie de cuestiones incluso cogiendo textos que están muy por debajo de lo que yo creo que hay que hacer porque usted me hablaba de cuál es el modelo de eh bildu

de la necesidad de romper con la lógica secuencial que hace que los mercados

a partir de ahí probablemente en este debate no por el tiempo que me queda pero en cualquier otro estoy dispuesto a con todo tipo y lujo de detalles cuál es la propuesta política de eh bildu no es que me interese especialmente la de el pnv pero podríamos también confrontarlas y por eso yo he cogido un texto de profesores universitarios y es bien cierto lo que usted ha señalado es doscientos más hirurehun yo he hablado de los vascos

que están vinculados a universidades que no están en euskal herria pero en cualquier caso por supuesto que nos vamos a poner detrás de la pancarta lo que yo no entiendo es que esto suponga un elemento

tal vez tal vez pueda ser eso en cualquier caso usted me señala también

insisto no confunda los prejuicios con la ideología y además

para señalar cuál es el carácter de las políticas que estos señores que van a venir el lunes a bilbao están aplicando y qué consecuencias directas dramáticas está teniendo sobre la ciudadanía sobre la ciudadanía de euskal herria y sobre la ciudadanía europea es una consecuencia que toma forma en paro en exclusión en marginación en precariedad en desahucios en pérdida de la dignidad en pérdida de cualquier horizonte vital solo por eso solo por eso creo que no da lugar a que me hable de prejuicios y en cualquier caso podríamos hablar de ideología

dedicada o destinada a contentar a los que mandan y lo sabemos

y por eso no nos han invitado a ese foro el lehendakari aquí dijo que como teníamos que abrir la mente estábamos invitados a ir pero a nosotros no nos ha llegado ninguna invitación es cierto que probablemente no nos llegue invitación porque se demuestra que el lehendakari es un convidado un artista invitado y por eso nos molesta doblemente que

se preste ha estas cuestiones porque creemos que no está representando el sentir mayoritario de la ciudadanía y nos decía que para relanzar euskadi para proyectarla no hay que rechazar a nadie no mire sí sí hay que rechazar a mí no me gustaría que el lehendakari acudiera a un congreso de la entrangueta si se celebrara en bilbao en donostia o en gasteiz o de la mafia o de la camorra no me gustaría que el lehendakari representara a euskadi

a las que no hay que estar dispuesto y a las que incluso creo que asistir es manchar el nombre de la institución y no porque lo diga yo sino porque creo que hay decenas de miles de personas que no entienden esa presencia y para terminar porque veo que me quedan solo escasos segundos le diré

dice algo así como hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero pero te vuelves soberbio con tus hermanos de tu pueblo eskerrik asko matute jauna

perdone que le diga pero el problema es que soy pequeñita le pareceré que salgo encogida

al natural no es que salga encogida ningún complejo ningún complejo

no le tengo nada que perdonar estamos acostumbrados porque es el adjetivo calificativo que a usted más le gusta poner al pnv una y mil veces utiliza usted el mismo independientemente de lo que hagamos o digamos matute jauna aurrekoan

bien a nosotros lo que nos gustaría es que al margen de explicar nos lo dieran escrito que lo tuvieran ustedes bien escrito y pudiéramos saber efectivamente cuál es su modelo realmente alternativo el modelo económico y que nos lo puedan pasar prieto jaunak aurrekoan

señor matute a pepe mujica presidente de uruguay que a mí me merece y además me parece un personaje digno de estudio con

desarrollo de determinadas políticas sociales muy interesantes y además con un perfil una figura

le preguntaron una vez sobre venezuela sobre hugo chávez y sobre maduro

tuvo un valor que a usted ni se le supone ni se le espera desde luego a la hora de referirse

habla desde la radicalidad del converso del que tiene que demostrar en determinadas filas que su conversión

matute romper a marras con aquellos que tienen secuestrada nuestra soberanía lo dicho

que desde ese punto de vista se la entendemos y se la pasamos en cualquier caso señora gorospe me parece que yo no he dicho en esta cámara

nunca me he referido al pnv como aldeanismo político salvo hoy

llevan haciendo un ejercicio de aldeanismo político con relación con este importante evento que se celebra el lunes

y le puedo asegurar que no tiene ningún afán peyorativo más allá del descriptivo y le he explicado por qué hace simplemente

creo que cuarenta y ocho horas el portavoz del gobierno vasco se ponía de perfil con este evento cuando le preguntaban los periodistas sobre este acto decía poco más o menos oiga que esto no va con nosotros

ni tan siquiera ha sido capaz de decir que es un buen acto para euskadi para nuestras empresas no ha sido capaz de decirlo ha dedicado su intervención a justificarse con relación con estos señores y por eso por lo que le digo que dónde está el partido nacionalista vasco

el discurso político de bildu que nuestras empresas están encantadas que nuestro tejido industrial y empresarial está encantado con el evento que va a haber el lunes

que se va a debatir se va a reflexionar y se va a hablar sobre las cuestiones que les afectan en directo y en primera persona

los que se benefician porque cuanto mejor les vaya a nuestras empresas

cuanto mejor les vaya a nuestras empresas más empleo se crea y eso es algo que no se lo he oído decir ni a usted ni al gobierno vasco y es algo que lamentamos

cuantas veces podamos cuantas veces seamos capaces traeremos actos como el que va a haber el lunes a euskadi no le quepa ninguna duda porque creemos que es bueno para euskadi para los vascos y para nuestro tejido empresarial

se conoce como la pobreza energética la incapacidad de satisfacer las necesidades de un hogar

al concepto últimamente tan utilizado como pobreza energética hoy veintisiete de febrero

y hay empresas energéticas que están tramitando algún expediente para cortar la luz o el gas a algún ciudadano vasco

venimos a analizar qué podemos hacer desde este parlamento para que ningún vasco se quede sin suministro energético esa es la pregunta que queremos responder los socialistas vascos

que puede llegue tarde asumimos la responsabilidad que seguro nos corresponde como esperamos que todos los que estamos aquí también la asuman porque todos sin excepción hemos tenido o tenemos responsabilidades en las instituciones incluida la acción de oposición así que hoy

que no tienen unas mínimas condiciones en sus hogares porque no pueden hacer frente a su factura de la luz o del gas

no hemos previsto que una sociedad con un paro insoportable y con unos salarios cada vez más bajos mientras subía el precio energético podía derivar en esa situación

a tiempo es que incluso en épocas menos dramáticas en datos macroeconómicos también había bolsas de población que se estaban encontrando con dificultades nos ha pasado en otros asuntos lo hemos vivido con los desahucios y aunque aún de forma insuficiente hemos reaccionado para poder poner trabas a que nuevas familias sean desalojadas

con la ley de vivienda que el grupo socialista ha traído a esta cámara también llegamos tarde a las cláusulas abusivas que se producían en la contratación de productos financieros y como con los desahucios

y poner obstáculos para que se reproduzcan en el futuro llegamos tarde todos por tanto también en afrontar la pobreza energética pero nuestra voluntad la de los socialistas vascos es llegar y ser capaces de poner medidas en marcha

ni de echar balones fuera huyendo entre todos del y tú más queremos fijar posición que este parlamento defina los puntos clave que se deben tener en cuenta y que para nosotros son los siguientes primero que se fije ya

que tanto daño está haciendo en las economías familiares y a la competitividad de las empresas que se implante un sistema de precios más justos

que se establezca un suelo social reconocido como derecho vital para dar solución a las situaciones de pobreza energética y a la angustia de muchas familias que no pueden pagar sus facturas y por último que se busque un gran acuerdo sobre el modelo energético de españa para las próximas décadas porque esto nos debiera de competer a todos

y también de que el gobierno del partido popular escuche a aquellos que no pertenecen a su partido político pero esa inacción no puede dejarnos a los demás en la pasividad es lo que contestó

que en euskadi no tenemos competencias para abordar esta situación

discrepamos nos sorprende la abdicación en la reivindicación del autogobierno por parte de los representantes del partido nacionalista vasco pero además de no entenderlo sobre todo discrepamos

los poderes públicos vascos en el ámbito de su competencia impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y podría añadir las competencias sanitarias las de vivienda las de asistencia social o la de defensa de los consumidores hay vías por las que podemos transitar

no podemos legislar sobre energía lo sabemos pero sí podemos legislar o tomar decisiones administrativas sobre suficiencia energética en las viviendas sobre garantías sanitarias de quienes ahora no pueden pagar sus facturas o sobre los derechos de los consumidores cuando por causas sobre venidas

y es que ya lo hemos hecho en otros asuntos cuando ha parecido interesarnos el gobierno vasco se ha mojado cuando el gobierno de españa impuso el regapo farmacéutico y dejar fuera de cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles el gobierno de patxi lópez hizo un decreto

el constitucional le dio la razón sobre los inmigrantes y tiene pendiente de resolver lo relativo al copago pero incluso en este caso hemos encontrado otra vía para resolver el problema arrastras por cierto al gobierno actual le costó más de medio año entender que nuestra sociedad no quiere que ningún ciudadano se quede sin medicinas por no poder pagarlas insistió mi grupo por los resquicios del reglamento del parlamento

rectificara su posición no queremos ahora que ante la pobreza energética ocurra lo mismo que dilatemos decisiones argumentando falta de competencia genérica porque también

hasta que empecemos a ofrecer soluciones por eso en la iniciativa que proponemos a debate en este parlamento reclamamos al gobierno vasco

que parece que no lo quiere hacer no resuelva las cuestiones legislativas básicas concrete medidas y sea valiente algo que por cierto ya han hecho otras comunidades autónomas cataluña comunidad autónoma en la que algunos se miran cuando el tema interesa

por el que se prohíben los cortes energéticos entre noviembre y marzo a las personas en situación de vulnerabilidad económica

y en diez días comunique su situación a los servicios sociales un sistema rápido sencillo

andalucía presentará su propuesta concreta en junio está elaborando un informe

está muy bien que el gobierno presente todas las alegaciones para impedir que las reformas energéticas perjudiquen aún más a empresas y particulares aquí el viernes la consejera tapia pero creemos que debemos ser más ambiciosos el estatuto nos encomienda velar por mejorar las condiciones de vida de los vascos

lo que repercute en la salud y por tanto tiene que ver con competencias sanitarias vascas

miles de vascos que no puede atender sus compromisos de pago de facturas

miles de vascos que a duras penas preservan un techo bajo el que vivir pero que nos las pueden mantener a unas mínimas condiciones de habitabilidad

y en esta cámara hoy estamos setenta y cinco vascos que no podemos permanecer de brazos cruzados

soluciones y dejar de mirar a madrid cuando parece que no interesa tomar responsabilidades así que por nuestra parte sin eludir nuestras responsabilidades estamos dispuestos a hacer viables esas soluciones como en algún otro debate se le ha dicho a este gobierno para eso sí nos va a encontrar

si tienen que aprobar algún decreto también colaboraremos no prejuzguemos la solución concreta esperamos que el gobierno vasco utilice los recursos técnicos y jurídicos a su disposición para hacerlo posible en lo que tiene que ver con las enmiendas que no hemos firmado como todos los parlamentarios aquí presentes han podido comprobar es verdad que en el grueso de las enmiendas que planteaban los diferentes grupos parlamentario a la totalidad podemos estar de acuerdo en el fondo

era fundamental que el gobierno vasco asumiera un compromiso no podíamos pasar por firmar un acuerdo en el que todo fueran exigencias al gobierno de españa máximo responsable

echando balones fuera y como me puedo imaginar la respuesta que me va a venir y ustedes no hicieren y ustedes no hicieron

les explicaré que como sigamos en políticas de reproches el país dejará de avanzar nada más muchas gracias eskerrik asko

parece mentira pero ha ocurrido esto es básicamente para llamarles la atención a ustedes

voy a decir porque efectivamente estamos hablando de un tema muy serio y es que en el siglo veintiuno en euskadi y en españa

de la pobreza en general y efectivamente en la euskadi de hoy en ese modelo euskadi que habitualmente suele defender el lehendakari

pasa frio en sus casas por lo tanto es un asunto de extraordinaria importancia en el siglo veintiuno en euskadi y en españa

si paga la factura de la electricidad o paga otra cosa

o paga otras necesidades básicas y fundamentales lo cierto es que el alza de los costes de la energía y en españa en concreto de la electricidad

de personas afectadas en españa hay uno coma cinco millónes de hogares que no reciben ningún tipo de ayuda pública y evidentemente esto no viene del cielo esto es consecuencia de una pésima política energética sobre todo de los gobiernos recientes del señor rajoy

que son los responsables del mayor alza proporcional y neta del precio de la electricidad en toda europa en los últimos

en otros países lo cierto es que no solo no se ha producido un alza de los precios de la energía sino que incluso han bajado y por lo tanto y ante este hecho deberíamos preguntarnos qué es lo que hemos hecho aquí qué ha ocurrido aquí para que consigamos ese círculo vicioso perfecto

la factura eléctrica que pagan las familias y por qué la política energética

en penalizar el ahorro la eficiencia y el autoconsumo la pobreza energética evidentemente ya se ha dicho no es otra cosa que la consecuencia material de la pobreza en sí es consecuencia del paro es consecuencia de los escasos

es consecuencia del alza de los precios de la energía pero es consecuencia sobre todo de los recortes sociales contra los ciudadanos no recortes sociales

contra los ciudadanos y la falta de políticas sociales y ante esta situación hay que hacer

sino poner deberes al gobierno al gobierno de españa y también al gobierno vasco no somos no éramos muy partidarios nosotros de hablar de pobreza energética preferíamos hablar de pobreza en general pero en todo caso hay que reconocer que el

europeo ha introducido este concepto por lo tanto hablamos de pobreza básicamente hablamos de desigualdad hablamos de exclusión social y dentro de todo ello el problema de la energía la falta de calefacción la falta también de acceso a la información

relevante otros países nos ganan por goleada en este tipo de cuestiones y en políticas sociales se trataría un sistema gubernamental de ayudas públicas para los sectores con rentas más bajas en españa no lo hay sabemos que euskadi está mejor en ese sentido pero también hay mucho donde avanzar pero en todo caso en españa no lo hay y si nos comparamos con muchos países europeos estamos muy alejados cualquier cosa por lo tanto menos ignorar el problema

ni otros ya se ha dicho antes por algún otro portavoz los desahucios la exclusión social la desigualdad a determinados problemas los gobiernos llegan

llegan claramente tarde se trata de que aunque estemos llegando ya demasiado tarde

cualquier cosa menos ignorar el problema ni sacrificarlo todo por cierto para alcanzar el objetivo sagrado de reducir el déficit público

se trata de solucionar este y otros problemas en lugar de vender cifras económicas

en fin nosotros evidentemente compartíamos en general la propuesta planteada por el grupo socialista pero a pesar de eso como suele ser habitual en estos casos hemos introducido en nuestra propia enmienda en la que proponíamos también instar al gobierno de españa a procurar un gran acuerdo

sobre el modelo energético y a elaborar y presentar en el congreso cuanto antes un plan energético nacional a largo plazo

autonomía energética seguridad del suministro viabilidad y competitividad

a tomar medidas para hacer frente a la pobreza creciente que sufre la ciudadanía

y más en concreto a definir un suministro energético básico y que este sea garantizado por el estado como un derecho básico que es básicamente lo que hemos defendido también recientemente

y instábamos también proponíamos instar al gobierno a comparecer en sede parlamentaria cosa que finalmente no se ha incluido en ninguna enmienda transaccional porque no la ha habido comparecer en sede parlamentaria cuanto antes antes del treinta de junio para exponer

a la denominada pobreza energética las empresas

las empresas deben servir a sus accionistas se dedican básicamente a eso y nos parece correcto y nos parece bien y está bien que les vaya bien pero nuestra obligación es exigir a los poderes públicos que sirvan a los ciudadanos

enmienda transaccional vamos a votar finalmente la propuesta original del grupo socialista creo que es una iniciativa justa

necesaria basta con leerla puede ser mejorable pero plantea un asunto de enorme gravedad y por lo tanto pensamos que en esta ocasión no podemos mirar para otro lado tenemos que mirar a madrid mirar al gobierno de españa para que actúe cuanto antes pero también al gobierno vasco porque tiene también mucho que decir

vamos a votar la iniciativa original ya digo nos parece justa y necesaria gracias eskerrik asko maneiro jauna

y los costes energéticos siguen subiendo y perjudicando

necesitamos una ley de medidas para prevenir la pobreza energética

una ley en la que todos los partidos estábamos de acuerdo el partido nacionalista vasco también todos menos el partido popular una ley sencilla que definía la pobreza energética

y no la tenemos en el gas ni con el natural ni con el propano ni con el butano también

esto se debatió el diecisiete de diciembre en el congreso de los diputados y esta ley la seguimos necesitando

es cierto también que tres días después el veinte de diciembre

presenta esta moción esta proposición no de ley en todas las comunidades autónomas

en las islas canarias en euskadi o en cataluña pero es cierto que aquí en euskadi nosotros tenemos un modelo propio y un modelo propio que hemos sabido ejecutarlo

no sé si habremos llegado pronto o habremos llegado tarde pero desde hace dieciséis años lo tenemos no se lo digo yo ahora mismo en febrero de dos mil catorce se ha publicado por la fundación de cajas de ahorros funcas y en su informe dice que euskadi cuenta además

y el índice de pobreza económica más bajo el estudio constata por tanto que en el conjunto de españa existen diferencias considerables entre las comunidades lo que supone que habrá que priorizar distintas políticas dependiendo de la situación de cada autonomía

modelos muy distintos en españa y en euskadi porque en euskadi qué es lo que hacemos que es pobreza energética no deja de ser más que pobreza

que sus gastos mensuales superan a los ingresos y de esto señorías de pobreza y de proteger a las familias vascas y lo llevamos haciendo muchos años a través de un esfuerzo conjunto de todas las administraciones públicas desde los servicios sociales de los ayuntamientos pasando por las diputaciones

coordinados cooperando todos juntos me dirán que la pobreza energética es nueva y yo les digo que no que aquí a través de las ayudas de emergencia social

los gastos de la energía y podemos ver en lo que es el artículo cuarenta y cuatro de esta ley

los gastos de energía agua es decir

llevamos dieciséis años trabajando no sé si hemos llegado pronto o tarde pero dieciséis años por lo tanto el gobierno vasco de urkullu como el de lópez como el de ibarretxe o como el de ardanza trabajan han trabajado y trabajarán

y aquí podíamos poner un ejemplo señora rojo sí se acordará como exactamente hace tres años

sufrimos aquellas facturas desorbitantes del gas canalizado de propano en núcleos rurales

donde las facturas llegaban desde los novecientos hasta los

pues ahí en ese caso también la ciudadanía vasca estuvo protegida a través de las aes con el gobierno de patxi lópez

que en aquella época sí que es cierto que también se gobernaba en españa y podíamos haber hecho algo con el bono social pero bueno no voy a por no entrar en ese debate no voy a entrar porque creo que le digo que el gobierno de patxi lópez también lo hizo bien así como el resto de gobiernos con el tema de las ayudas de emergencia social

energética y para esta pobreza energética bien cuánto es lo que nos implicamos como gobierno vasco bien en dos mil trece hemos invertido trescientos veintidós millónes de euros

de vivienda invertimos en proteger a las familias tres veces más

en ayudas de emergencia social el gobierno vasco sin contar ayuntamientos y diputaciones en el dos mil trece invirtió diecinueve millónes de euros seis veces más que la siguiente comunidad autónoma por lo tanto aquí ya no hablamos de percepciones sino de realidad de datos y no le voy a dar datos del gobierno vasco sino vamos a utilizar datos

en el que dice que el índice que sirve como medidor del bienestar del país el producto interior bruto por habitante euskadi es la comunidad autónoma que está la primera este índice que lo ha publicado ahora en enero de dos mil catorce euskadi se mantuvo a la cabeza de españa por pib por habitante

de la media estatal y de los veinticinco mil seiscientos euros por habitante que registró de media la unión europea

euros por persona es decir más que la media europea pero creo que vamos a ir al índice que más nos importa que es el de los hogares de euskadi

estadística nos dice que son los que tuvieron la mayor renta disponible bruta por habitante

nos dice que con veinte mil quinientos cincuenta y ocho euros por habitante un treinta y tres por ciento más que la media estatal

pero es decir que euskadi está a la cabeza y un estudio publicado

a parte de que nos diga que la trayectoria cíclica de la economía vasca es mucho menos volátil que en la mayor parte de las regiones y que su población activa alcanza también el mayor nivel educativo de españa

lo que el estudio afirma es que euskadi ocupa la primera posición en cuanto al nivel de desarrollo humano

y bienestar material y que cuenta por ejemplo con los menores niveles de desigualdad y el índice de pobreza económica más bajo del país luego esa es la realidad de euskadi que hay que seguir trabajando claro que sí lanean jarraitu behar dugu noski baietz

señor maeztu y es cierto y podemos seguir trabajando y como usted bien sabe porque es también concejal de ayuntamiento

a la hora de los indicadores pues tenemos definido o intentando sectorizar por alquileres intereses créditos otros gastos de mantenimiento

definir claramente cuáles de esos gastos de mantenimiento de esas ayudas de emergencia social que tenemos que aportar a nuestras familias cuál es la parte que afecta a la pobreza energética pero aquí no nos puede comparar con el resto de comunidades autónomas porque aquí tenemos un modelo propio

por lo tanto yo creo que en esa línea y yo creo que ya también desde hace dieciséis años aquí no necesitamos ninguna candela eskerrik asko eskerrik asko

buenos días señorías señora rojo comparto la preocupación como no podía ser de otra manera de su iniciativa de que hay un número de personas que se encuentran en una situación difícil

pobreza energética pero no puedo compartir de ninguna manera el que el gobierno de españa esté impidiendo dar solución a este problema

todo tipo de medidas de carácter social con el objetivo de garantizar la sostenibilidad

porque la prioridad del gobierno del partido popular no es solo luchar contra la pobreza energética que también sino además garantizar en su conjunto

del estado de bienestar pues esa es la mejor forma de proteger a los más desfavorecidos o a los que están en riesgo de exclusión social algo

señorías ya que según el ine hay un ligero descenso de la tasa de pobreza

que mis argumentos los datos que yo aporte quizá

no los van a tener ustedes en cuenta porque tristemente el juego de la política

estéril e ineficaz pero créanme que el gobierno está haciendo y trabajando arduamente desde hace mucho tiempo

mayor protección social lo primero voy a destacar la reforma laboral sí la reforma laboral ya que no hay mejor política social para luchar contra la pobreza y la exclusión que construir un nuevo modelo de relaciones laborales que frene la destrucción de empleo

y favorezca la competitividad y lo segundo señorías tenemos un plan nacional de acción para la inclusión social dos mil trece dos mil dieciséis una dotación nada más y nada menos de ciento treinta y seis mil millónes de euros con doscientos cuarenta medidas

de riesgo de exclusión social y tercero y no último españa ha conseguido que el veinte por ciento del fondo social europeo

hablemos del origen de esta pobreza porque el causante de la situación energética que tenemos el causante de que las tarifas eléctricas sean tan elevadas no es el gobierno del partido popular

esta es una situación heredada tenemos un sistema eléctrico con enormes desequilibrios acumulados durante los ocho años de gobierno socialista porque señorías hay muchos conceptos para definir la pobreza energética ustedes han utilizado algunos pero hay muchas definiciones pero una es muy clara

en términos de precios de energía después de la aplicación de determinadas medidas

exactamente en la dirección contraria a la que se tenia que haber ido

y que no querían eludir la responsabilidad me alegro que no la quieran eludir pero hablemos claro las tarifas eléctricas se incrementaron un sesenta y tres por ciento

y cuando el partido popular dejó el gobierno en dos mil cuatro el precio de la energía estaba situado en la parte media baja de la unión europea durante la etapa socialista

el sesenta y seis coma veintiséis por ciento es decir tuvo un incremento anual del seis coma nueve por ciento y para las pequeñas y medianas empresas

éramos la tercera energía más cara de europa solo nos superan irlanda y chipre y a eso hay que añadirle el déficit tarifario

como resultado de unas políticas equivocadas esa era la situación íbamos camino del precipicio por ello seamos consecuentes por favor y llama la atención que ahora cuando la subida media anual es tan solo del dos coma tres por ciento cuando la factura de una familia media con dos hijos esto es el precio de la energía

ha tenido un incremento del tres coma dos por ciento frente al seis coma nueve por ciento casi el siete como pueden ustedes comprender que tuvo de media aquellos

y entonces es ahora cuando ustedes hablan de pobreza energía no es antes cuando hablaban

que haber tenido esa preocupación y ahora también en el año dos mil trece en el que ha habido una

de solo el cero coma tres por ciento que es el incremento menor que ha habido desde el año mil novecientos

es decir ahora y no antes es cuando ustedes plantean estas cuestiones pero bueno vamos a ver más vale tarde que nunca de verdad

es algo absolutamente determinante y solo ha habido tres ocasiones en los que se ha disminuido el precio de la electricidad en relación al ipc y ha sido octubre de dos mil doce

enero de dos mil trece que se redujo un cuatro coma dos por ciento y abril de dos mil trece que se redujo un seis coma dos por ciento

dos años de gobierno del partido popular y yo siento que ustedes no mostraran esta preocupación cuando el gobierno anterior estaba poniendo en marcha una determinada política energética

subiera casi de media como ya les he dicho un siete por ciento eso sí que era eso sí que era no caminar sino impulsar la pobreza energética

aquellas políticas nos han pasado factura nunca mejor dicho

el pasado nos ha hipotecado para veinticinco años y como no había crisis se apostó por unas energías que no estaban maduras que se primaron desmesuradamente y se

en fin por no hablar de las primas a renovables que ya esto ya

unas primas absolutamente excesivas pero bueno señorías con este gobierno la situación es dura es muy difícil pero se está afrontando

se está actualizando la normativa de contratación de suministro y sobre todo se mantiene y se mejora la protección a los consumidores vulnerables ya que se mantiene el bono social bono social que en estos momentos está afectando a más de dos coma cinco millónes

y desde este grupo le pedimos al gobierno que siga con el proceso de reformas estructurales que empezaron a poner en marcha hace dos años y que sigan que sigan con la profunda transformación de la normativa del sector eléctrico que como estamos viendo va en la buena dirección a pesar de lo que digan algunos porque esa

contribuye a la reducción de la factura eléctrica y por tanto contribuye eficazmente a luchar contra la pobreza es verdad que las medidas del gobierno del partido popular

suponen un coste para todos los actores del sistema eléctrico para todos señorías para todos pero es más verdad que si hubiéramos seguido por la senda del gobierno anterior nuestro sistema eléctrico hubiera quebrado y el recibo de la luz en vez de estos porcentajes que antes les decía hubiera tenido que subir por encima

eso sí que hubiera contribuido a aumentar la pobreza energética y eso señorías se ha evitado con las políticas que está implantando
el gobierno del partido popular muchas gracias eskerrik asko iturmendi andrea

señora iturmendi papelón el suyo pero desde luego atreverse a decir

de julio aquí el noventa por ciento ha subido el recibo de la luz

porque en mí opinión sus reformas son las causantes principales de lo que está sucediendo le diré

porque sino el partido popular lo inventaría es una vergüenza asuman responsabilidades cuando un partido político es capaz de hacer autocrítica y usted avala la actitud oiga

unos hemos gobernado en unos momentos y otros gobiernan ahora esto es responsabilidad de todos el asumir responsabilidades por cierto la reforma laboral exitazo o sea y lo definiría como el éxito de los últimos tiempos lo aprueban sindicatos trabajadores

españoles hoy en día y continuando con el señor carro le diré señor carro

del responsable de la pobreza energética claro que no ha nacido la pobreza energética en el dos mil catorce los partidos socialista ha traído esta iniciativa a este parlamento de soluciones no le hemos dicho qué medidas concretas queremos no le estamos diciendo al partido nacionalista vasco en euskadi que hipoteque la política energética que entiende que tiene que hacer

de forma conjunta para poder dar soluciones a los ciudadanos usted ha hablado de diciembre de dos mil trece es verdad el partido socialista

la misma iniciativa es la diferencia entre un partido nacionalista y un partido federal

la propuesta es abierta no dice que haya que hacer mismo en ceuta que en euskadi que en madrid que en la rioja

de nivel empresarial de nivel económico y de las políticas que cada gobierno entiende que tiene que hacer aplique las medidas pero que las aplique por lo tanto no se nos ocurre decir que euskadi

pero es que ocurrió otra cosa en diciembre de dos mil trece el partido socialista

y el partido nacionalista dijo no dijo no y no hubo declaración institucional entre otros porque el pnv no quiso firmar lo que ahí se decía

que queríamos aprobar en la declaración institucional porque tampoco era

una barbaridad que un gobierno no pudiera aceptar y dice usted euskadi tiene modelo propio cierto y tiene noventa mil personas con dificultades para pagar la tarifa del gas y de la calefacción

y es verdad que gracias a estas dos herramientas hay familias que son capaces de poder solventar sus dificultades económicas

de nómina la única nómina que llega a esa familia no recibe ni rgi

lo normal es que tenga que pagar una hipoteca y le llegará una factura bimensual entre doscientos y trescientos euros dígame usted

que tiene que hacer frente a gastos cotidianos como todas las familias no entra en ciertas dificultades para acabar estas facturas es a ese grueso de la sociedad a la que nos referimos ojalá nadie tuviera que acudir a las aes y a las rgis pero hay muchas familias vascas

y que no pueden pagar la factura que no pueden encender la calefacción y que no pueden duchar a los niños con agua caliente entonces por supuesto que el pnv no es el responsable ni el señor lópez ni el señor ardanza ni el señor ibarretxe pero es un problema que está hoy

y somos los políticos de hoy los que tenemos que buscar soluciones eso es lo que el partido socialista pretendía y desde luego no pretendemos comparar euskadi con ninguna comunidad autónoma lo que sí que pretendemos es que aquí se asuman responsabilidades

cuando justificó el decreto de compensación del copago en euskadi por ejemplo hay cuatrocientos mil pensionistas que reciben menos de dieciocho mil euros tampoco recibirían aes tampoco recibirían rgi

con muchas dificultades a la hora de llegar a pagar las facturas

y debe ser responsabilidad de todos el llegar a soluciones no acusando a zapatero señor iturmendi porque tampoco voy a acusar yo que fue el primero que tomó la decisión de nacionalizar muchas empresas que ahora de aquellos barros estos lodos

que es a lo que juega siempre el partido popular en todos los debates ustedes gobiernan españa y ustedes gobiernan euskadi

en este caso a los ciudadanos vascos por lo tanto unos no miren hacia otro lado y otros por favor
no busquen al indeseable e insensible zapatero que ya les digo menos mal que existe porque sino no sé de qué hablarían las tribunas eskerrik asko rojo andrea

eskerrik asko presidente andrea bien por contestar en primer lugar

al señor carro que habla de un modelo propio de hacer frente a la pobreza y en este caso

energética es un error señor carro es un error hablar de la pobreza energética y querer simplemente reducirlo todo a las ayudas de emergencia social y a la posibilidad que existe con esas ayudas o la renta de garantía de ingresos

primero de todo porque no solo tienen que ver las condiciones sociales que también y desde luego es prioritario en estos momentos a una serie de familias o de personas que se encuentran en una situación dramática por medio de las ayudas sociales que puedan hacer frente a las facturas de la luz del agua o del gas y evitar cortes

de la situación social nos encontramos con un modelo energético y una factura energética que ha subido un cuarenta y seis por ciento

cuatro años sin contar el tarifazo de finales del dos mil trece y una factura del gas que ha subido un treinta y dos por ciento hay personas que están en riesgo de ser pobres energéticamente y de hecho o son pobres

que jamás cobrarán ayudas de emergencia social ni renta de garantía de ingresos

enfocarlo por ahí es cuanto menos un poco cínico también hablar de un sistema propio de respuesta social

en dos mil trece se subió de diecisiete a diecinueve millónes y tanto eudel

que era totalmente insuficiente y sí es cierto conozco los servicios sociales de base de algunos ayuntamientos vaya y pregúnteles por cuánto se ha multiplicado la necesidad de hacer frente a los pagos de facturas del gas

años y si está siendo suficiente con las partidas del gobierno vasco para las ayudas de emergencia social pero es que además de ser un error

tener cierto punto de cinismo sabiendo cuál es la realidad de las ayudas de emergencia social resulta también un poco chocante el ejercicio de mirarse el ombligo que ha hecho usted aquí yo no sé lo que pasa en el resto del estado sé que según un estudio que ha hecho en el año dos mil trece la diputación foral de gipuzkoa

solo en gipuzkoa están en riesgo de sufrir pobreza energética por eso pedíamos

que se haga un estudio para saber cuál es la situación en la comunidad autónoma vasca porque no es solo un tema de ayudas de emergencia social de ayudas sociales es un tema mucho más global

global pero es que en todo esto yo creo que también hay por parte del partido nacionalista vasco un ejercicio de querer escurrir el bulto porque está el modelo energético y está el papel que ha tenido su partido en ese modelo energético y están muy recientemente lo que ha hecho su partido en el debate de la ley

del sector eléctrico solo hay que leer en las actas

y ver cómo ustedes votaron a favor de un articulado porque habían negociado con el partido popular

que se cerrara garoña también se podía haber negociado que no se gravara el autoconsumo energético podían

que a final de mes a quien tiene que elegir entre comprar comida o ropa o pagar la factura de la luz no se le corte

pero no negociaron nada de eso negociaron una rebaja de los peajes

hizo palmas con las orejas de acuerdo pero mientras tanto miles de personas y también aquí tienen que encender velas y al cesar lo que es del cesar y al pnv lo que es del pnv mientras

y otras encienden velas pero cómo le llaman ustedes a eso

frente a populismo pues en este caso nadie les obligaba

y a dejar apartado otra serie de consecuencias que esa ley del sector eléctrico trae también a esta comunidad autónoma besterik ez eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu anderea verá partido socialista y verá portavoz

y de bildu se equivocan no poniendo en valor el modelo de protección vasco se equivocan porque esa es la última herramienta

para estar protegida y para no caer en esa miseria que usted ha dichjo para que no tenga que poner esa vela

en no proteger ese modelo y en defenderlo porque seamos sencillos con todo lo que me ha dicho cuando una de esas familias

y se le pregunta usted qué quiere cobrar

o quiere usted un trabajo digno todas las familias aquí por lo menos las vascas con orgullo lo que quieren es un trabajo digno y cómo vamos a tener un trabajo digno si el gobierno vasco no hace un trabajo como lo lleva haciendo desde hace muchísimo años y no solo el gobierno de urkullu sino el de ibarretxe el de ardanza e incluso el de lópez

cómo no va a defender a las empresas que necesitamos las familias no viven del aire o es que su gente quiere vivir del aire seguro que alguno sí seguro que alguno sí

pero las familias lo que quieren es trabajo entonces el partido nacionalista vasco defiende a esas industrias

de esta manera estas familias no tendrán que pedir esa indemnización podrán invertir esos dineros en otras cosas eso es lo que estamos trabajando entonces sí que es cierto que como primera medida lo que necesitamos es que el estado haga esa ley de política

esa ley de protección porque es cierto que la pobreza energética

y si tuviesemos esas defensas en el estado no tendríamos que estar aquí en el gobierno vasco porque aquí siempre estamos y llevamos dieciséis años estando

deberían de haber protegido y me alegro porque le noto que está usted bastante fresco hoy porque desde el domingo que envié la transaccional

perfectamente bien lo cual me alegro eskerrik asko eskerri asko carro jauna

gracias presidenta lehendakari señorías yo comprendo señora rojo porque es complicado

el papelón que tienen ustedes porque en esta cuestión yo le decía el otro día al señor zaballos

que cuando se tiene el tejado de cristal es complicado

ustedes son los responsables de la actual situación energética en españa y comprendo que le duela

el gobierno del partido popular ha cogido el toro por los cuernos permítanme la expresión ahora es verdad que era

a que lo sea y las medidas que ha puesto en marcha el gobierno popular están encaminadas a mejorar la capacidad de pago de las personas que están afectadas por la pobreza energética

propiciar una mejora en la eficiencia energética de la eficiencia energética podemos hablar largo y tendido

que a la eficiencia energética le destinó cuarenta y cuatro coma tres millónes de euros que mire como tengo poquito tiempo

pero realmente créanme que fue una actuación digna luego se arrepintió se arrepintió también de las renovables

a la compra de bombillas fluorescentes cuando en el mercado ya había bombillas de otro tipo pero bueno

pero sin salirme de la cuestión decirles que como ustedes hablaban y mencionaban a las empresas yo comprendo

tiene que ser duro que ahora en este momento recordar que este gobierno es el que ha puesto

los que graban el almacenamiento de los residuos nucleares que antes no se pagaban con ustedes

del dominio público de los ríos que antes no lo pagaban o sea nuevos impuestos y nuevas medidas

a las empresas del sector no estaban más contentos con ustedes pues yo creo que sí realmente este gobierno está haciendo lo que tiene que hacer

tan terrible que le ha tocado afrontar y la mejor protección al consumidor vulnerable la mejor medida para luchar contra la pobreza energética

es reducir la factura y es lo que está haciendo el gobierno del partido popular

ustedes con sus actuaciones créanme que ha sido es duro decirlo no me gusta decirlo no me gusta yo les aprecio a ustedes créanme ustedes lo saben

pero el pasado su pasado nos ha hipotecado en cuestión de energía eléctrica veinticinco años seis coma nueve por ciento de subida anual tres en este momento y el precio de las renovables las primas a la renovables

es un mal balance yo lo comprendo señora rojo pero no se altere tanto créanme que

enmienda de adición lehenengo bai bozkatu dezakegu

señorías de nuevo en este parlamento tratamos el aeropuerto de foronda y lo hacemos porque

que llegan cada día sobre este aeropuerto no pueden ser más desalentadoras desde hace dos años como todo el mundo sabe este es un aeropuerto que cae en picado es un aeropuerto que fomento decidió

ir poniéndolo en ese pelotón de aeropuertos que están más cerca del cierre que de su utilidad logística simplemente para ilustrar esto en este año

que creo que confirman la necesidad de que este parlamento tome en consideración lo que está pasando y tenga preocupación por el futuro

de la climatología cómo este aeropuerto estando dotado

incluso del país no era capaz de albergar el desvío de vuelos cuando no lo podían hacer en otros aeropuertos de nuestro entorno fundamentalmente de loiu

imposible este año en estos todavía dos meses sin terminar

que ese hache doce que le hacía funcionar solamente por las noches al aeropuerto de vitoria se va a reconvertir en en el cual los fines de semana no estará operativo

y hoy mismo hemos sabido que al mismo tiempo que en uno de los hospitales de vitoria en el hospital de santiago se avanza

poder producir trasplantes este aeropuerto que hasta ahora era una referencia en todo el norte de españa para precisamente utilizar esa capacidad logística

órganos para poder trasplantar tampoco podrá estar operativo es decir

en algunos aspectos con los que desgraciadamente nos enfrentamos a otros que hacen casi inviables o imposibles que

estas potencialidades puedan funcionar por lo tanto frente a eso todo lo que aparece

son planteamientos a medio plazo sabemos bastante de eso

objetivos con operadores de turismo con vuelos a un lugar hacia otro con compañías con las que se estaba en conversación

hemos sabido que se quiere programar algún vuelo para baleares

pero todo a medio plazo todo sin saber con mucho detalle

porque hasta ahora cada vez que se han dado noticias en positivo en ese sentido cuando ha llegado el tiempo de materializarlas

las promesas o los compromisos son muy vagos y las realidades

estamos perdiendo más capacidad de servicio más capacidad de competir más capacidad de dar logística desde el aeropuerto de foronda esto exige por parte de este parlamento y de las fuerzas políticas de este parlamento que velemos por que

esa logística del país vasco que la componen tres aeropuertos esa logística que tiene que tener un servicio directo

pero también sobre la capacidad del país vasco para entrar y salir de él para ser un lugar de comunicación

y porque tenemos las mejores instalaciones porque sabemos hacerlo porque este es un aeropuerto que si se le deja trabajar podrá trabajar y podrá hacerlo mucho

y lo que sin embargo no tiene por qué ser aceptado como pérdida por parte de la mayoría de este parlamento sabemos

unanimidad pero sí sabemos que hay una mayoría en este parlamento así lo hemos suscrito en una enmienda transaccional con el partido nacionalista vasco

sí que hay una mayoría en este parlamento que no queremos que este aeropuerto pierda capacidad pierda competitividad pierda servicio y desde luego no queremos resignarnos realidad que con el gobierno actual de españa es posible pero que sin embargo con gobiernos anteriores no era así porque operaba las veinticuatro horas y porque a pesar de las dificultades que pueda tener el aeropuerto que tenía que tuvo y que tendrá este aeropuerto

fundamental es un aeropuerto imprescindible si queremos competir como aeropuerto de carga principalmente como aeropuerto de carga pero también si queremos que todos los demás servicios que están ligados a esta potencialidad

hemos planteado una iniciativa que como digo tiene en estos momentos una transaccional un apoyo a raíz también de la iniciativa que planteó bildu y que han sido sumadas para su tratamiento

en el que se dice que el gobierno vasco negocie con el gobierno de españa reestablecer la actividad de las veinticuatro horas

del día durante los trescientos sesenta y cinco días del año que se mantenga el puesto discreción

que se repongan todos los medios necesarios y por tanto el mantenimiento de la plantilla instalaciones servicios operatividad potenciación y rentabilidad del aeropuerto de foronda

y potenciación del aeropuerto que contemple vuelos de viajeros

vuelos de carga vuelos especiales de contingencias de emergencias etcétera también se plantea en esa enmienda transaccional

que se inicien las conversaciones y las gestiones necesarias para proceder a la transferencia de la competencia aeroportuaria algo sobre lo que ya nos hemos

anteriores con el fin de que la comunidad autónoma del país vasco pueda desarrollar de manera efectiva en el aeropuerto de foronda la competencia en materia de aeropuertos

el denominado comité de coordinación aeroportuario entre el estado y la comunidad autónoma del país vasco a fin de definir la estrategia aeroportuaria aplicable en euskadi

no necesita retoques el aeropuerto de foronda si queremos que siga existiendo necesita una actuación integral esta posición política este planteamiento

reclama esa posición integral esa actividad integral del aeropuerto de foronda y por eso espero que además de los que ya firmamos esta enmienda transaccional si de verdad se está apostando por que este aeropuerto recupere su personalidad y su capacidad operativa haya más grupos

turno introducir algunas cuestiones para analizar con un grado de realismo suficiente la situación de lo que ha sido de lo que es

de foronda en primer lugar me gustaría recordar cuál es la situación que tenía este aeropuerto en la gestión de lo que debe ser un aeropuerto eficaz y que existía tan solo hace unos meses hace muy poco tiempo

ciento treinta ciento cincuenta trabajadores pagados

pagados por todos mirando al techo esta era la situación que teníamos en el aeropuerto de foronda

porque la gestión de un aeropuerto no se mide por el número de trabajadores que tenga

y sobre todo cuál es la rentabilidad operativa que tenga un aeropuerto como este por tanto a mí me gustaría saber si hay algún grupo parlamentario que a día de hoy considere que el aeropuerto de foronda estaba bien gestionada con ciento treinta trabajadores mirando al techo muchas horas del día

esta es una pregunta que no es baladí porque parece que

interpelaciones y de muchas propuestas es retrotraerse a la situación anterior por lo menos habrá que empezar haciendo una autocrítica como mínimo colectiva para establecer

bien gestionado con ciento treinta personas que no tenían actividad por decirlo de otra manera

y era necesario incorporar un plan distinto un plan mejor un plan más eficaz bien hoy ese plan está sobre la mesa

en relación a si la manera en la que se ha explicado todo esto

en relación a si los plazos entre la situación original que creo que es claramente negligente en lo que tiene que ver con la gestión pública y la actual

pero incorpora un ingrediente muy importante que aquí se pasa siempre sobre la mesa el nuevo plan de funcionamiento del aeropuerto de foronda uno

y segundo se hace con paz social con un acuerdo con los trabajadores esta es una cuestión que tampoco es una cuestión menor

apuntaré un asunto que también me parece especialmente relevante el aeropuerto de foronda no es un aeropuerto que nadie en este parlamento y nadie en ningún otro sitio

más bien cuando ustedes aportan los datos solo hay que pedirles

medio lleno que es como está no medio vacío cuando la portavoz de bildu establece un dato que es cierto

y además hay que decirlo con orgullo el aeropuerto de foronda

solamente en carga en el mes de enero ha tenido un incremento del catorce por ciento respecto a enero del año dos mil trece

fue el mejor año de los últimos cinco qué hace pensar que el aeropuerto de foronda no está siendo especialmente bien gestionado en una competencia que es especialmente relevante en lo económico como la carga yo creo que habría que empezar por decir eso pero hay una cuestión adicional

la cuestión que preocupa y que también especialmente ocupa a todas las administraciones la decisión que se ha tomado

con acuerdo con los trabajadores que no es un asunto menor es decir y hacer que el aeropuerto de foronda sea un aeropuerto operativo las veinticuatro horas del día de manera que

cualquier vuelo de pasajeros pueda utilizar el aeropuerto de foronda siempre

los trescientos sesenta y cinco días del año y esa es la realidad del acuerdo

evidentemente no con ciento cincuenta trabajadores sino con treinta y con paz social con acuerdo con los trabajadores

es un aeropuerto que está despuntando en materia de carga y es un aeropuerto que atiende vuelos las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco

para que la plantilla se pueda reajustar o alguien en esta cámara pretende que haya como en la vieja época de la gestión

una situación en la que los trabajadores estén con los brazos cruzados mirando al techo o mejor dicho

porque ese es el problema que parece que preocupa algunos especialmente cualquier vuelo de pasajeros que se programe en el aeropuerto de foronda se atiendeen el aeropuerto de foronda

esto si se consolidan o cualquier otro vuelo que se pueda establecer para el aeropuerto de foronda

entra y cualquier vuelo esporádico o espontáneo con un preaviso de cuatro horas entra en el aeropuerto de foronda por tanto decir la verdad

y después del acuerdo con los trabajadores es un aeropuerto operativo las veinticuatro horas eso sí no puede atender en diez minutos un vuelo desviado de loiu y yo me pregunto pero de quién es ese problema de quién es el problema

de loiu o de foronda de quién es el problema de que el aeropuerto de loiu tenga problemas para atender

y que cada dos por tres porque es un aeropuerto peor en esas condiciones técnicas

oiga se lo digo como vitoriano y como representante del grupo popular en esta cámara cuando quieran

foronda es un buen aeropuerto y tiene capacidad técnica para acogerlo siempre no habrá vuelos desviados de foronda a loiu salvo contadas excepciones hay muchos más

por tanto el problema no es foronda el problema es loiu

y quiero saber si hay algún grupo que quiere tener empleados funcionarios en foronda mirando al techo todo el mes del verano a ver

ese es el problema no el problema por tanto no es de servicio operativo del aeropuerto hoy

hoy después de una gestión difícil de explicar eso sí de ciento treinta trabajadores todas las horas del día

cualquier servicio por tanto foronda tiene todo el servicio atendido lo que no tiene es vuelos lo que no tiene es vuelos y entonces en ese momento si el diagnóstico es ese empezamos a ver un poco colorados a estos señores de aquí un poco colorados a estos señores de aquí un poco colorados a los de nuestra bancada

no por el color de su sigla que también sino lo digo con todo el respeto

un poco colorados todos porque si el problema no es de servicio sino es de tener vuelos por qué hay gestiones desde el gobierno vasco

porque hay dinero y lo hay y acabamos de hacer un acuerdo político institucional unánime

ya no es una cuestión de aena ya no vale coger la piedra y apuntar a ver a quien tiro de los diez de allí

resulta que si el problema no es de servicio sino que es un problema de vuelos

traer más vuelos o poner más dinero para traer más vuelos y entonces ese problema es un problema como mínimo compartido y me gustaría

a esas cuestiones alguien quiere revertir la situación a los ciento treinta trabajadores sí o no y alguien quiere

y con acuerdo con los trabajadores un aeropuerto operativo las veinticuatro horas sí o sí o sí o no

alguien no está en acuerdo en este punto me gustaría saberlo por eso de a transparencia en la posición de cada uno y luego eso sí

alguien quiere que el aeropuerto de foronda simplemente como se ha llamado sea un aeropuerto secundario un aeropuerto auxiliar o como ya se ha sugerido en el día de hoy

para eso no queremos foronda yo para eso no salgo aquí a defender foronda yo quiero mucho más

hemos dicho que queremos del aeropuerto de foronda un aeropuerto preferente preferente no es auxiliar ni es secundario ni es la pista auxiliar de la te cuatro

ya es un aeropuerto que tiene todas las posibilidades para atender las veinticuatro horas vuelos de pasajeros señores faltan vuelos

sí muchas gracias vaya por delante que no hablo como parlamentario

ni tampoco como donostiarra o como guipuzcoano sino como parlamentario vasco

los problemas que existen con una visión lo más amplia posible para a partir de ahí resolver

parlamentario vasco y trataré de explicar cuál es nuestra posición en relación a foronda nuestro aeropuerto pero que también es igual que lo es foronda los otros dos aeropuertos son nuestros

temporales que ha registrado durante las últimas semanas la cornisa cantábrica han vuelto a poner sobre la mesa la absurda situación que se vive en los aeropuertos vascos

el que mejores condiciones técnicas tiene es decir foronda fuera de servicio durante la mayor parte del día e imposibilitado para acoger los aviones que eran desviados desde loiu desde que en agosto del dos mil doce le quitó la catalogación de aeropuerto hache veinticuatro es decir la apertura durante todo el día

lo cierto es que foronda languidece de una forma más destacada que en tiempos anteriores cuando ya era de por sí notable ese estado vegetativo en el que malvivía desde que aena

la posibilidad de reducir el horario operativo de foronda lo cierto es que upyd se ha mostrado en contra de esta medida y ahí está en fin las iniciativas planteadas por upyd nos entrevistamos también varias veces con los trabajadores comparecencias y registramos distintas iniciativas para defender foronda no desde una visión localista sino desde una visión lo más amplia posible

foronda es imprescindible y puede jugar un papel absolutamente fundamental lo cierto es que la situación actual del aeropuerto es

al menos y lo cierto es que los últimos acuerdos habidos no permiten en ningún caso planificar una política real de vuelos que pienso que es lo que se necesita al principio se habló de excepciones y de flexibilidad para poder abrirlo para cuestiones puntuales o en días claves estas últimas semanas de temporal se ha visto que todo aquello eran promesas para intentar callar la boca a los trabajadores y a la oposición en estas últimas semanas ha sido ciertamente sangrante penoso ver cómo los vuelos desviados desde loiu en vez de aterrizar en foronda lo cual parecía ser lo más lógico a poco más de media hora en coche de bilbao las aeronaves se iban a barcelona madrid e incluso

a más de cuatrocientos kilómetros y a casi cinco horas del lugar al que querían

el aeropuerto de foronda es actualmente y creo que nadie puede cuestionar este hecho el que mejores instalaciones y condiciones técnicas de operación tiene de toda la cornisa cantábrica norte de castilla y león y alto ebro y el único de la zona que admite sin dificultad los aviones más grandes que vuelan

cuando se decidió el cierre el déficit de explotación de este aeropuerto en dos mil once fue de diez millónes de euros por lo que no se le puede hacer responsable de inflar el déficit anual doscientos veinte millónes de euros en dos mil once ni de la deuda total más de doce mil millónes de euros en dos mil once que tenía la empresa pública

desde el veintitrés de agosto de dos mil doce la empresa ha ordenado reducir el horario operativo a uno nocturno de solo doce horas

se eliminó también el puesto de inspección fronterizo que era necesario para admitir productos perecederos uno de los nichos importantes de negocio para la carga no olvidemos que

por el pescado que llegaba a él en su momento denunciamos que sospechábamos que se pretendía deteriorar intencionadamente un servicio público para promover a continuación su privatización alegando sin datos fiables mayor eficiencia y eficacia de la empresa privada a la pública es verdad que no tenemos ningún dato objetivo para mantener esa afirmación pero lo cierto

para salvar foronda no se están impulsando suficientemente todas las medidas necesarias para salvar foronda además se está favoreciendo otros aeropuertos cercanos ya se ha dicho

menos limitaciones o incluso se les ha favorecido como son los casos de zaragoza o burgos sin ninguna causa y sin que pueda decirse tampoco que se base esa decisión o esas decisiones en una política racional de las infraestructuras aeroportuarias a nadie se le escapa

están teniendo un gran impacto en la opinión pública a través de las informaciones recogidas en los medios de comunicación en fin a través también de las redes sociales por los propios

la terrible realidad en ocasiones de esos aterrizajes hechos al límite y el fuerte malestar provocado por los desvíos por lo tanto existe un problema un problema real de seguridad en el aeropuerto de loiu que no se puede ni se debe ignorar

como consecuencia de las cancelaciones y de los frecuentes desvíos de vuelos que deberían aterrizar en él nuestra alternativa es la complementariedad de loiu

el aeropuerto alavés debería seguir especializado en carga y se deberían explorar otros nichos de negocio aeroportuario además de intentar atraer

extremo que loiu no puede admitir por sus graves limitaciones que han quedado patentes en las semanas pasadas

con aviones de doscientos cincuenta pasajeros parece que es una prueba que se unirá a los vuelos

a las islas baleares en verano todavía no se sabe si esto finalmente va a ser así si aena permitirá estas operaciones en horario

estas medidas no dejan de ser parches o promesas y en nuestra opinión se necesita una planificación y una verdadera política aeroportuaria que coordine los aeropuertos

del norte de españa en una visión global y donde foronda por sus buenas características tiene mucho que decir se trata de abandonar posiciones localistas y defender una política racional de las infraestructuras

de distintos países europeos que incluso son capaces de compartir aeropuertos no ya comunidades autónomas o regiones sino países que comparten aeropuertos yo creo que esta es la vía alzar una mirada a lo general y proponer

racional de las infraestructuras que tenemos estamos convencidos de que el aeropuerto de foronda puede cumplir perfectamente las funciones de aeropuerto regional de larga distancia internacionales de referencia para la comunidad autónoma vasca e incluso también para comunidades vecinas también en vuelos y actividades de otro tipo mantenimiento de aeronaves escuelas de pilotos vuelo recreativo etcétera

de vuelos internacionales por ello presentamos una enmienda sencilla que pretendía decirle a quien tiene la competencia y está en su mano es decir

transferencias que vuelva a poner en servicio de forma inmediata a él aeropuerto de vitoria durante las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año que se recupere

puedan llegar vuelos con productos perecederos y que se involucre el gobierno vasco

en la elaboración de estrategias para hacer viable este aeropuerto no es que lo necesite como habitualmente suele decirse no es al menos solo eso sino que creo que lo necesitamos el conjunto de los ciudadanos y en breve sino la hemos registrado ya presentaremos una iniciativa en el congreso de los diputados de modo que fomento contemplen foronda como aeropuerto internacional por tener la localización

para poder convertirse en referente y si se quiere en preferente en el norte de españa y donde loiu evidentemente pueda también cumplir un papel absolutamente fundamental a nosotros ciertamente nos parece los más razonable y lo más sensato

nosotros estaríamos dispuestos a votar el primero de los puntos de esa enmienda de transacción creo que podemos coincidir en lo fundamental

comenzaré diciendo respecto al desvío de los vuelos de loiu que para nosotros es anecdótico y que tanto le preocupa al señor maroto y al señor maneiro aunque este último ya ha puesto algunas cuestiones

decir que no ha sido el partido nacionalista vasco el que ha tomado las decisiones de desviar estos vuelos

que es un aeropuerto de interés general del estado titularidad por lo tanto estatal

la que decide los desvíos y ustedes los de grupo popular tienen capacidad

por tanto son corresponsables de los desvíos de loiu señor maroto en cualquier caso

yo también soy alavés y lo que tenemos que hacer es revisar nuestros planteamientos trabajar por promocionar lo nuestro y ser más competitivos que nuestros vecinos

con otros territorios por mantener y mejorar su posición en el espacio territorial en este mundo globalizado que nos ha tocado vivir para ello para mejorar esta posición

particularmente las carreteras los aeropuertos y los ferrocarriles hace escasamente quince días debatimos en esta cámara sobre cuál es el papel que debe jugar el tren de alta velocidad y los ferrocarriles hoy nos toca hablar del aeropuerto de foronda y para ello debemos conocer cómo se halla situado cuál es la posición que ocupa en el modelo centralizado de gestiones de aeropuerto españoles

en volumen de carga la postura de nuestro grupo es sobradamente conocida porque ya la hemos expuesto desde esta misma tribuna hace escasamente un año y a la que me remito en su integridad por si alguien tiene curiosidad en conocerla en esencia

ambos dirigidos a quién tiene una enorme responsabilidad en lo que ocurre con foronda al gobierno de españa y al grupo político que lo sustenta en el primer punto se le pide al gobierno de españa que adopte las medidas para que el aeropuerto de foronda se halle plenamente operativo sin limitaciones de horario

de modo que pueda acoger vuelos de pasajeros y de carga y actuar también como aeropuerto de contingencia cuando las circunstancias así lo requieran en segundo punto demandamos que se proceda a la transferencia de los recursos necesarios para el ejercicio de la competencia aeroportuaria reconocida a la comunidad autónoma del país vasco en el estatuto de autonomía de gernika

recogidos en la enmienda de transacción y por eso la vamos a apoyar a nosotros nos hubiese gustado más incorporar

pero a algunos les ha entrado el vértigo en definitiva señorías pretendemos resolver los problemas y las cuestiones que impiden realizar una política aeroportuaria para euskadi intentar que no nos afecte la nefasta política estatal de implantación en los aeropuertos y la gestión que se hace de los mismos

ello nos permitiría eliminar incertidumbres para los potenciales usuarios del mismo las compañías aéreas de pasajeros y carga y nos hubiesemos evitado

no obstante y por no repetir argumentos expuestos desde esta tribuna quisiera tratar

en determinados ámbitos institucionales y también desde algunos partido políticos se cuestiona la bondad de que este aeropuerto

se pone en duda que ello suponga ventaja alguna para nuestros ciudadanos

en realizar un somero análisis sobre la situación de otra infraestructura de transporte

para poder comprobar los resultados que reporta una gestión realizada desde euskadi para valorar y contraponer lo que supone tener la competencia y realizar una gestión cercana frente a una gestión a distancia de una infraestructura ajena me refiero al caso de las carreteras señorías al respecto siendo diputado general de álava don fernando de la de ocariz antecesor seguramente de una ilustre parlamentaria que se sienta en esta cámara con nosotros

que la construcción y mantenimiento de puentes caminos y obras públicas que se realice en álava corren por cuenta de la diputación foral de álava

siendo esto importante para nuestro territorio en este mismo documento y esto es importante para euskadi

ya gozan de esa exención y textualmente dice que las tres provincias han de ser iguales señorías estamos hablando de algo que ocurrió en el año mil seiscientos cuarenta y cuatro pues bien desde entonces y hasta la actualidad año dos mil catorce

ha proyectado construido mantenido y mejorado la totalidad de las vías rodadas excepto autopistas en régimen de concesión mientras dure la misma que transcurren por nuestro territorio entre ellas se encuentran importantes vías como la actual ene uno que forma parte de una red europea de carreteras la conocida como e cinco

hemos decidido cuándo y cómo construir estas infraestructuras europeas infraestructuras de carreteras

debiera tomar buena nota del ejemplo de las carreteras por todo ello podemos afirmar con toda rotundidad que los vascos tenemos experiencia en la construcción y gestión de redes de comunicaciones europeas el grupo popular debiera explicar a los alaveses por qué no quiere que nuestras instituciones participen en la gestión del aeropuerto de foronda nuestro grupo sin embargo

con el fin de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos por eso trabajaremos para que las decisiones sobre foronda y el papel que debe desempeñar esta infraestructura se adopten desde euskadi sobre el papel del gobierno vasco en este asunto que apuntaba la señora beitialarrangoitia decirle que el gobierno vasco como indicó

que bajo el principio de un aeropuerto tres terminales establecerá las bases de una política

y un escenario en el que la cuota de participación del gobierno vasco en su gestión sea superior a la actual evidentemente este plan de gestión tendrá unas determinadas características si el aeropuerto es titularidad estatal o bien

a eso se ha dedicado este gobierno a revertir la situación creada

y el gobierno de españa sustentado por el partido popular ustedes son los responsables de la situación en que se encuentra foronda y por eso han de quedar claras las responsabilidades de cada administración

y al gobierno de españa y eso queda manifiestamente claro

pretendemos que se adopten las medidas adecuadas para que foronda se

sin estar sujeto a acuerdos puntuales con los trabajadores que por cierto

con el futuro del aeropuerto de foronda besterik ez eskerrik asko

en el año dos mil catorce la capital gastronómica pero está mal que se aproveche usted para intentar dar

porque esa no es una receta ni clásica ni moderna ni de cocina de autor ni de cocina antigua es una trampa como tramposa ha sido

en relación al baño de realismo que nos ha querido dar aquí diciendo que en foronda los trabajadores miraban al techo y que por lo tanto había que hacer algo si esto es verdad

usted con el señor oyarzabal con el diputado general y con alguien más en mayo del dos mil doce corrieron a madrid a decir que no había que cerrar

por qué no plantearon entonces aquello por qué no dijeron entonces que esto es lo que había que hacer porque sobraba plantilla y sobraba capacidad operativa en el aeropuerto de foronda no ustedes corrieron a sacarse la foto se llevaron a los periodistas se llevaron a los fotógrafos

eran capaces de parar aquello y no lo pararon obviamente

es más ustedes nos abroncaron en público a los socialistas por en alguna institución cercana a esta señalar que el ministerio de fomento quería pasar de las veinticuatro a las doce horas diciendo que nosotros solamente traíamos noticias tristes y al final nos comimos el hache doce esta es la realidad este es el baño de realismo por cierto

porque el empleo público yo creo que hoy en la realidad en la que estamos viviendo es más necesario que nunca y en vez de preocuparse por recortar empleo público habría que preocuparse por darle ocupación efectiva

en el aeropuerto de foronda ahora algunos que miraban para la mesa por ejemplo en el sector bancario en ese que hemos tenido que rescatar

miles de millónes en ese que usted conoce bien con las siglas de bankia en ese sí que había empleados muy bien empleados muy bien pagados que no se necesitaban para nada y que crearon la tensión y la tensión económica que han creado en este país por lo tanto en fin con alguna historia a las espaldas sería mejor

cuando se habla del empleo público de su ocupación efectiva de la necesidad de que haya un sector público que sostenga ese empleo

en ese baño de realismo hoy usted quizás queriéndose aplicar el realismo asimismo no ha dicho ni pamplona del hache doce bueno pamplona igual navarra

pero no ha dicho absolutamente nada del hache doce y yo le digo a usted porque eso está

se cierra los fines de semana y le pregunto para qué necesitamos

dónde van a estar la plantilla de foronda para que en cuatro horas se puedan movilizar

aneja a la aeropuerto de foronda en fin usted sabe que el

de organización del trabajo que de oferta de un aeropuerto usted sabe que si un aeropuerto no tiene una oferta amplia a aquellos que quieren operar con la logística que ofrece ese aeropuerto lo más probable es que deje de formar parte de sus aeropuertos cabecera o de sus aeropuertos

en fin ya que es el alcalde de vitoria ya que el aeropuerto es el aeropuerto de vitoria yo creo que haría mucho mejor en intentar despejarnos dudas sobre qué va a hacer su gobierno a partir del tres de abril sobre qué va a hacer su gobierno para establecer una política efectiva de operatividad de este aeropuerto que intentar irse

mire los desvíos del aeropuerto de loiu no es un problema de loiu es un problema de ese aeropuerto vasco con tres terminales esa logística vasca con tres terminales que tiene que dar el país vasco y que en vez de darla el país vasco la da la rioja o la da zaragoza

la pregunta es por qué pueden ir hasta allí y no se pueden quedar aquí pues es muy sencilla la respuesta
porque se han cargado la operatividad de ese aeropuerto eskerrik asko prieto jauna

se acaba de producir en este momento mientras estábamos en el debate un acuerdo entre el partido popular

lo siguiente en concreto es una enmienda que se ha transado

sobre una enmienda sesenta y ocho del grupo popular está firmada

y el portavoz del pnv y ha sumado los votos del grupo socialista en el congreso de los diputados

del portavoz del grupo nacionalista siento

es muy amplio y es también de amplio espectro

muy relevantes este acuerdo pp pnv y psoe dice en relación a foronda que hay que continuar trabajando en la mejora de la eficiencia aeropuerto de vitoria

garantizando su sostenibilidad y un servicio adecuado

de las compañías y usuarios es decir esto afecta estamos hablando de la operatividad veinticuatro horas cuestión que aludía en el primero de los turnos tener el aeropuerto operativo veinticuatro horas no es tenerlo esperando a que se desvíe un vuelo en loiu eso es un problema distinto

lo recogemos con los brazos abiertos no en detrimento de loiu

es la primera parte del acuerdo la segunda tiene que ver con aumentar los servicios momento en función de la demanda lo vuelvo a leer aumentar los servicios en cualquier momento en función

lo que estaba diciendo en el primer turno lo que hace falta no es ampliar el servicio que ya está ampliado

traer más vuelos a foronda no es un problema de servicio

de vuelos es como digo la novedad en el día de hoy porque este acuerdo como digo

de diputados en el congreso en esta

tiene que ver con esa propuesta de resolución transada entre el partido popular y el pnv y que tiene el voto también del partido socialista que

en relación a foronda más vuelos no más operatividad porque ya la tiene y es una conclusión por cierto bastante certera

este texto en relación a lo demás yo creo que todo lo que podamos decir está fuera de lugar hay un acuerdo como digo completamente amplio y de lo que se trata es de que juntos lo más juntos posibles siempre como hemos hecho hasta ahora

traer más vuelos traer más vuelos a un aeropuerto que ya es operativo las veinticuatro horas yo

presto mi máxima colaboración a la consejera y a cualquier otro

con este ese objetivo que hoy se ha cerrado en madrid también lo tenemos que impulsar

eskerik asko presidente andrea muy brevemente también sabíamos que

se estaba negociando porque nuestro grupo en madrid había presentado unas enmiendas

pero todos sabemos el alcance que tienen estas propuestas en un debate de política general por tanto

cómo y cuándo se lleva a la práctica señorías isiltasuna mesedez
entonces veremos señor maroto si la fiesta sigue o si llega el comandante

el planteamiento de nuestro grupo sigue vigente al respecto en el sentido de trabajar y reclamar para euskadi

que no es poca cosa y por tanto seguiremos trabajando al respecto

por puntos algún problema orduan bozkatuko dugu lehenengo puntua